las recomendaciones realizadas por el ararteko y compartimos el objetivo de mejorar las futuras ofertas públicas de empleo después de analizar el informe valoramos positivamente su contenido una vez realizado el pertinente análisis jurídico nos hemos comprometido a incluir sus aportaciones

uno la colaboración la transparencia y el grado de información ofrecida tanto por el ivap como por osakidetza que en palabras textuales del informe

y plena dos el informe no cuestiona las bases operativas sobre las que se organizó y llevó a cabo la oferta pública de empleo unas bases pactadas con los sindicatos

para esclarecer las sospechas de irregularidades y culminar la ope con garantías cuatro el informe

tanto psicométricos como el informe de propuestas de nuevas medidas

de hecho afirma textualmente que los informes psicométricos

tengan una base motivada y razonada y define

como una serie de propuestas y recomendaciones textualmente

e interés asumimos plenamente la necesidad de debatir entre los agentes implicados las medidas de mejora para un proceso tan complejo como es la selección de profesionales en ese mismo sentido entendemos las referencias realizadas por el informe a la temporalidad del empleo pese a que el informe no aporta dato alguno para sustentar esta recomendación si bien

sí resulta oportuno recordar que este gobierno y el anterior hemos realizado una clara apuesta por el empleo público y de calidad

se han convocado dos ofertas públicas de empleo una en dos mil quince y otra en dos mil diecisiete que suman cuatro mil quinientos treinta y cinco plazas

hemos hecho todo lo posible dado que este es el máximo que permite la tasa de reposición fijada por la normativa básica del estado este mismo va a ser el criterio a mantener en el futuro aprovechar al máximo

agente guztiekin elkartu eredu berri bat lantzeko eta proposatzeko estamos dando cumplimiento a los compromisos adquiridos ante este parlamento el pasado cinco de febrero

de la dirección de recursos humanos configurando una unidad específica y permanente para la selección de personal presentaremos en el plazo previsto el modelo con las propuestas para mejorar las futuras ope y mantenemos nuestro compromiso la actual oferta pública de empleo con todas las garantías en definitiva vamos a seguir trabajando para mejorar el servicio público

les aseguran que ni tan siquiera en dos mil veinte se va a cumplir el estatuto de gernika y ustedes se muestran como encantados y encantadas en vez

de una relación de igual a igual con el estado español que recoge el nuevo estatus que estamos trabajando al que usted mira de perfil

urtea ere amaitu da superabitarekin para cuando vengan mal dadas dio sailburuak mal dadas para algunos vienen desde hace mucho tiempo

en su balanza ha pesado más la obsesión contra euskal herria bildu que las necesidades de la ciudadanía han preferido quedarse sin presupuestos por el puro cálculo electoral

con la lectura única sin tener acuerdos de antemano nos pedía esta semana que nos posicionáramos no nos pide que nos posicionemos señor urkullu nos pide que le digamos qué vamos a votar si vamos a votar sí si vamos a votar posicionarse es dar la oportunidad de decir ante este tema qué es lo que propone euskal herria bildu y usted sabe qué es lo que propone euskal herria bildu sabe que estamos de acuerdo con la subida salarial de los y las trabajadoras públicas

los recortes para las familias que más lo necesitan no estamos

con los recortes en materia de pensiones y usted lo sabe le hemos dicho una y otra vez que no queremos recortes que queremos que se cumpla la ley se acuerdan ustedes

estos recortes lo que decía el partido nacionalista vasco miren no solo existe el plan a se ha demostrado que existe el b pero también existe el cien y el quinientos y si hay voluntad política

más allá de la que refleja el debate parlamentario la acción ejecutiva se basa en un programa en unos planes estratégicos

responsable y eficaz para responder a los retos y objetivos de país esta es nuestra prioridad la suya es subrayar que el gobierno está en minoría parlamentaria

de hecho nada ha cambiado en el seno del gobierno en estos dos últimos años nuestra puerta está siempre abierta ayer mismo así se demostró

y habernos advertido de la imposibilidad de pactos la realidad sin embargo es que es posible alcanzar acuerdos esos acuerdos los vamos a seguir trabajando

ambas debido a la escasa capacidad del gobierno para negociar y buscar apoyos para sus propuestas entre la oposición cómo va a afrontar el lehendakari y su gobierno las consecuencias negativas que acarrea una prórroga presupuestaria a la vista de estos fracasos

le hemos oído hablar de acuerdos como si por el hecho de mencionarlos

fueron incapaces de llegar a ningún acuerdo planteando unos presupuestos continuistas y antisociales

el fin de semana pasado se autoproclamaban el gobierno del acuerdo cuando han demostrado su incapacidad para llegar a ninguno y sin embargo han demostrado

una ley de medidas urgentes que no solo abordaba el aumento del salario de las personas funcionarias sino que quiso además vendernos

públicamente nuestra predisposición a apoyar el aumento del dos coma veinticinco al funcionariado a principios de enero

sin embargo prefirieron tomar como rehenes a los y las trabajadoras públicas para intentar sacar otras medidas sin intentar el acuerdo y solo basadas en la imposición qué es para usted esto qué es para usted un acuerdo ordeno y mando un acuerdo señor lehendakari es una decisión tomada en común

ahora intentando corregir su metedura de pata se han planteado o nos han planteado una ley troceada en tres y con nula autocrítica

quien tiene que sacar adelante sus proyectos de ley vuelven a demostrar que son un gobierno irresponsable que juega con los intereses de muchas familias y usan además a los funcionarios como rehenes sin buscar ningún tipo de consenso ni de acuerdo pero nosotros elkarrekin podemos vamos a actuar

con la responsabilidad con la que no ha actuado el gobierno por eso el próximo jueves elkarrekin podemos va a ser útil

porque tenemos compromiso de mejorar la vida de las personas así que le digo que haremos realidad mediante nuestra abstención

es de justicia que recuperen su poder adquisitivo y sin embargo no es justo ni necesario

posibilitaremos con nuestra abstención también crítica

porque no vamos a obstaculizar la reversión del recorte del siete por ciento pero seguimos considerando esencial que vuelva a referenciarse al smi la gente en euskadi merece tener la seguridad

con la aportación de las instituciones tenemos

ante la que cada cual tendrá que posicionarse con la reversión del recorte completo por último no podemos apoyar el aumento de los conciertos

de la enseñanza en la escuela concertada lehendakari

permítame un consejo deje las artimañas a un lado y empiece a negociar

porque si no lo único que van a demostrar es que ni saben ni pueden gobernar en minoría eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

aurrekontua quiero recordar que ya advertí que la prórroga presupuestaria no iba a ser un drama

vamos a plantear todas las medidas posibles porque contamos con un presupuesto de ingresos superior al del presupuesto del año dos mil dieciocho la regulación de la prórroga en el titulo noveno de la ley de régimen presupuestario permite

señor martínez usted conoce la tramitación parlamentaria usted conoce realmente la técnica parlamentaria usted conoce y respeta los informes de los letrados de la cámara señor martínez mire la primera medida ha sido tramitar tres proyectos de ley de medidas urgentes con objeto de solventar algunos problemas

y atendiendo lo que es el reglamento del parlamento vasco señor martínez hemos propuesto

cómo es esto de que se va a abstener usted porque no le gusta que nos subamos el sueldo nosotros y ustedes y ustedes

actualizar los modelos de los conciertos educativos e incrementar la cuantía de la renta de garantía de ingresos muy especialmente de manera complementaria para las personas pensionistas más necesitadas una segunda medida va a permitir adecuar la dotación presupuestaria de los programas de subvenciones así como de los gastos e inversiones

la tercera medida permite la adecuación presupuestaria para ejecutar todos aquellos proyectos necesarios para el desarrollo de las políticas públicas

la financiación de estas medidas señor martínez se realizará en base a las aportaciones previstas para este ejercicio o mediante remanentes de tesorería de conformidad

en definitiva vamos a adoptar todas las medidas que permitan seguir mejorando los servicios que ofrecemos a la ciudadanía y además

nuestro objetivo es lograr que los efectos de la prórroga presupuestaria no afecten negativamente a la ciudadanía eskerrik asko

el estatuto de autonomía del país vasco dispone que la organización el régimen y el funcionamiento de las instituciones establecimientos penitenciarios

que debe ser asumida por la comunidad autónoma del país vasco el programa de gobierno de esta legislatura incluye la conclusión total del contenido de esta transferencia pendiente

que no lo hacía desde hace siete años acabando así con una situación de sequía en cuanto a las transferencias el pasado veintidós de enero recordamos que el gobierno de españa confirmó su intención de continuar el desarrollo del autogobierno en los términos que establece nuestro estatuto siguiendo la doctrina del tribunal constitucional en relación con los asuntos pendientes el grupo socialista tal y como ha venido defendiendo en esta cámara de una forma reiterada considera que es una muy buena noticia que se normalicen los cauces de diálogo entre las dos administraciones para continuar

para resolver las cuestiones técnicas que hagan posible los traspasos

que se haya cuestionado esta transferencia y que se hayan querido hacer interpretaciones totalmente ajenas a la literalidad de nuestro estatuto de autonomía el pasado viernes señora consejera como usted muy bien sabe una delegación de esta cámara pudimos visitar el centro penitenciario de zaballa

y los que dependen de la administración autonómica porque esto hay que recordar que es así desde el año ya dos mil once cuando entonces socialista en euskadi y socialista en el estado consolidaron un modelo de gestión coordinada en materias sanitaria educativa de orientación laboral

ese objetivo que marca hoy nuestra legislación y personalmente durante la visita pensé y comprobé el compromiso que tienen estos funcionarios y en cómo se han volcado en

cuando cumplan las penas que les han sido impuesta por los tribunales puedan reinsertarse y también la verdad es que pensé en el desprecio el acoso el insulto

y hasta los asesinatos que han padecido y pensé en qué razones tan injustas fueron y esgrimieron quienes los mataron y los apoyaron y pensé como pensamos los socialistas que ese trabajo que desarrollan los empleados públicos de instituciones penitenciaras ahora de forma coordinada y en un futuro de forma integrada algunos los ponen en cuestión con argumentos que nada tienen que ver con esta trasferencia

lo que dicen nuestro estatuto señora san josé sabemos que su departamento ha venido trabajando con esta previsión porque ya nos lo ha adelantado en varias ocasiones en esta cámara y sobre ello usted sabe que vamos a debatir próximamente en un pleno monográfico de política penitenciaria por eso mi grupo cree que es un momento oportuno para que la consejera de trabajo y justicia que está al frente del departamento que se va a hacer cargo

y que nos dé su punto de vista con respecto al alcance que tiene este traspaso

señora castelo egun on guztioi como miembro de este celebro que por fin sea posible establecer un cauce de dialogo leal entre las administraciones central y vasca para poder mejorar nuestro autogobierno y hacerlo

teniendo en cuenta la doctrina constitucional y nuestras previsiones estatutarias es una voluntad que las dos formaciones que suscribieron el acuerdo de gobernabilidad

que lamentablemente no se ha podido materializar hasta el momento por la falta de receptividad del anterior gobierno de españa y que ahora va a ser posible

y creo que tiene un inmenso valor político que responde a lo que la ciudadanía

la práctica del diálogo para resolver las diferencias políticas y hacerlo desde la seguridad y el respeto a las leyes respecto a la transferencia sobre la que me preguntas señora castelo le digo que el departamento de trabajo y justicia está preparado para asumir esas nuevas competencias de gestión

desde mi primera comparecencia en esta cámara dejé claro que una de las cuestiones a las que nos íbamos a dedicar era hacer un diagnóstico certero de cuál es la realidad de nuestras cárceles

el modelo que queríamos poner en marcha con las nuevas herramientas que íbamos a tener a nuestra disposición para ello hemos contado con la inestimable ayuda de expertos en la materia a los cuales les agradezco su labor es importante saber para qué se quieren las competencias en este caso las queremos para completar un modelo de gestión penitenciaria integral

que quienes se han saltado las normas y han sido privados de libertad

asuman su responsabilidad y el daño causado por nuestra parte vamos a poner los medios para que puedan completar un itinerario que les permita su reinserción en la sociedad

tenemos experiencias de éxito desarrolladas a partir de las competencias asumidas hasta el momento nuestro sistema de justicia juvenil aun con las marcadas diferencias entre un sistema y otro es una referencia por otra parte el convenio firmado en dos mil once entre las entonces consejera de justicia idoia mendia y la secretaria de instituciones

nos ha permitido ser la única comunidad autónoma a parte de cataluña

a tal fin creamos el servicio vasco de gestión de penas que nos ha proporcionado una idea clara de qué podemos y qué debemos hacer para tener éxitos en la meta de conseguir que euskadi reduzca su población reclusa mejore los ratios de no reincidencia los programas gakoa o el de sensibilización y concienciación para delitos para la seguridad vial son buenas muestras de ello

competencial en el que vamos a desarrollar nuestra labor con los medios materiales y humanos que nos sean transferidos es decir los actuales estos días hay quien está poniendo en duda porque la negaron en su momento la conveniencia de esta transferencia

que una aplastante mayoría de la ciudadanía vasca considera positiva la transferencia de esta competencia las penas las imponen las y los jueces serán ellos quienes tomen las decisiones sobre el régimen de cumplimiento en cada caso

las herramientas necesarias para cumplir con el mandato constitucional de reinserción social de todas formas tendremos ocasión de profundizar más en esta cuestión cuando
se sustancie el pleno monográfico previsto eskerrik asko eskerrik asko

efectivamente estamos en años de crecimiento estamos en años de recuperación y

pero también le quiero trasladar en mi inquietud mi preocupación porque efectivamente tenemos la tasa de paro más bajo de españa y estamos creando empleo

la recuperación para recuperar los niveles que teníamos antes de la crisis o si vamos a conseguir que esa recuperación se traduzca en ese que no puede ser otro el objetivo

teníamos un número de ocupados superior al millón de personas en el país vasco

que el de la media nacional creamos el uno coma seis y la media en españa

del tres por ciento fíjese si usted piensa lo que ocurría en euskadi antes de la crisis entonces había treinta y nueve mil setecientos quince perceptores de rgi hoy todavía a pesar de que estamos bajando en número estamos en cincuenta y cinco mil por tanto estamos muy lejos de estar impulsando un ritmo que nos permita recuperar

que hemos perdido y a mí eso y a usted también le tiene que preocupar hay datos que también me inquietan de la evolución de empleo del año pasado se destruyó empleo en el sector privado y por tanto la recuperación de empleo ha sido protagonizado por un tirón fuerte en el sector público cuando vemos la evolución del empleo en el sector privado observamos con preocupación el descenso también del empleo

también en la industria y datos que algunos son sorprendentes también sabe usted que en los tres

en la comunidad autónoma y que el cincuenta y seis por ciento de los empleos que se crearon el año pasado fueron ocupados por extranjeros por población extranjera población

menos del seis por ciento de la población ocupada en el país vasco

y sociales que ha propuesto este año y trajo aquí un proyecto de ley estaban ustedes muy preocupados por su aprobación

trocear el proyecto de ley para que la oposición trocee su voto gobierna usted a cachos pero realmente también gobierna con un modelo social que nosotros no podemos

refieren a medidas dirigidas al sector público sectores dependientes del sector público de todo su margen económico de este año

más pues ya se ha gastado este dinero en esto va a emitir menos deuda

yo calculo que no menos de cien millónes de euros para apoyar algo al sector privado que está sufriendo porque nuestro modelo social cuando

la retribución que más va a subir es la de los perceptores de ayudas sociales vamos a actualizar y a recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos pero no tomamos ninguna medida para un sector privado que está en contracción y que no es capaz de generar empleo pues ese modelo desincentiva

haga un giro y que haga un giro en su política económica y en su política social

más abierta y una política claramente más liberal que reduzca impuestos que haga que pueda empezar a crecer el número de emprendedores porque un año más en el país vasco descendió el número de autónomos yo eso es lo que le pido y esa es mi crítica no bloquear la acción de gobierno sino que usted de verdad apueste por un modelo social

tensión creativa y que sea menos intervencionista y dependiente exclusivamente de la evolución del sector público

para que pongan en contraste sobre la mesa cuál es el modelo social que tiene este gobierno

del partido popular a ver si llegan a ese punto en común de que reconozcan que no es el modelo social ni de uno ni del otro es el modelo social propio de este gobierno en todo caso mire reitero la valoración de la tendencia y la tendencia que es positiva

porque creo que superada la recesión es necesario subrayar que es el quinto año consecutivo de crecimiento y creación sostenida de empleo en euskadi en el año dos mil dieciocho

en el diez coma dos por ciento según los datos de y prefiero tomar esta referencia por prudencia

resultados algo más positivos la evolución de las personas que cotizan a la seguridad social se mantiene a buen ritmo hace cinco años estábamos en el mínimo de ochocientos setenta y cinco mil personas y hoy alcanzamos las novecientos cincuenta y tres mil no las novecientos treinta mil señor alonso es cierto que los datos del mes

y vamos a conocer una evolución con altibajos pero la tendencia es positiva y el objetivo de reducir el paro por debajo del diez por ciento para el año dos mil veinte es alcanzable y

si sumamos fuerzas avanzaremos más en un objetivo que compartimos mire tenemos mucho por hacer en creación de empleo y en la mejora de la calidad del empleo usted habla de un giro este año vamos a destinar

tenemos seis programas en marcha desarrollo local veintiuno millónes emprendimiento veintidós millónes empleo juvenil treinta y cinco millónes formación sesenta y uno millónes inserción laboral setenta y seis millónes y planes renove ochenta y cuatro millónes

este año vamos a destinar seiscientos cincuenta millónes a inversión

y ciento ochenta a proyectos de industrialización y además seiscientos millónes a avales empresariales nuestro objetivo es incentivar catorce mil quinientos nuevos empleos este año un objetivo

mi valoración por lo tanto es positiva sobre todo por una realidad incuestionable lograr más y mejor empleo es el objetivo prioritario por lo que veo de todas las instituciones agentes económicos y sociales empresas y sociedad vasca en su conjunto

vamos a poder reducir el paro por debajo del diez por ciento del año dos mil veinte este es el compromiso conjunto del país y desde luego del gobierno crear más empleo de más calidad y poner bases sólidas para consolidar valga la redundancia el empleo del futuro euskal ekonomiaren garapena positiboa da

porque algunos según su propia terminología hoy han celebrado su propio

pero bueno vamos al tema mila bederatziehun eta hirurogeita bian

ez dela egin eta beste aldetik dagoeneko ere eragile guztiak kontra dauzkala y sobre la renta de garantía de ingresos tenemos que decir que han conseguido algo también meritorio

las han desindexado de cualquier referente objetivo que suponga precisamente eso una garantía ustedes han sometido quitando esa indexación a la renta de garantía a una subasta anual ligándola a los presupuestos y poniendo de forma injusta en el ojo del huracán

este país es un país grande en muchos sentidos y también es un país fuerte en términos socio económicos si lo comparamos con el contexto global

más desarrolladas del mundo no todo es una catástrofe y no todo es un desastre pero evidentemente hay que hacer tres constataciones que creo que son muy claras hay graves problemas estamos mucho peor que hace diez años hace diez años la comunidad autónoma vasca tenía el ciento treinta por ciento de la renta media europea hoy hemos retrocedido

estamos muy por debajo del potencial que tiene este país

necesita un liderazgo necesita una ambición y alguien capaz de tomar el timón y llevar este país con visión estratégica

betetzeari uko egitea el secreto de la buena marcha o de la buena situación relativa de la economía vasca en el contexto global al que antes mencionaba

que son evidentes no es desde luego la gestión del partido nacionalista vasco

tener una mejor posición relativa pero también tenemos amenazas muy claras en ese terreno tenemos unas exportaciones de las cuales los cinco primeros productos

de la automoción un sector que está a la puerta de cambios disruptivos tanto por razones relacionadas con la transición energética como por la emergencia de nuevos competidores y ante eso

a un par de meses de las elecciones no ante eso hace falta una reflexión estratégica porque está amenazado por cambios disruptivos el sector sobre el que pivotan nuestra industria y nuestra economía nos hace falta impulsar una industria sí pero una industria avanzada y la industria a día de hoy la industria del país vasco solo

están empleadas en sectores de valor tecnológico alto

en la parte alta de la tabla el sector alto del componente tecnológico alto

francamente claramente por debajo de esa media europea podría seguir enumerando una serie de problemas tenemos a una universidad del país vasco

es una orden mendicante que cada año cuando vienen los presupuestos pasea a sus rectores así a ver si pueden completar esos presupuestos en vez de ser una institución mimada es una institución obligada a estar siempre pidiendo para parar los presupuestos tenemos a kutxabank protagonista del mayor proceso

en empresas industriales vascas de la historia de este país

en el sector del comercio tenemos empresas como euskaltel que se crearon con impulso público

por la prensa tenemos mucha serie de problemas pero tenemos una legislatura que ha llegado al ecuador ha llegado el ecuador ha aprobado usted tres leyes y dos de presupuestos carreteras y dopaje en el deporte ha pasado dos años largos pretende pasar el resto de la legislatura así pretende pasar una legislatura en blanco usted se ha apoyado en el partido socialista y el partido popular el partido popular no por el gusto del señor alonso sino porque desde madrid así se lo han impuesto

usted va a liderar los cambios que este país necesita usted va a buscar las alianzas que este país necesita o usted va a condenar a este país a pasarse

preocuparse por el posicionamiento internacional por ejemplo de nuestro país creo que los indicadores en los que usted se basa no son los indicadores actualizados permítame que le haga la referencia a que actualice sus indicadores o los resultados de los indicadores actuales por la necesidad de responder a los retos de futuro que se nos presentan me habla usted del empleo de la industria del medioambiente de la educación el sistema de protección

me habla de que nuestro posicionamiento internacional futuro va a depender de las decisiones que se tomen hoy efectivamente señor casanova

de la misma forma nuestro posicionamiento internacional de hoy depende de las decisiones que este gobierno y los anteriores adoptaron ayer y todos los días anteriores precisamente en relación al posicionamiento internacional

y el contenido del documento visión del futuro de europa que el gobierno había aprobado en marzo compartimos la preocupación por lo que hemos de ser en el ámbito de la unión europea

internacional estamos haciendo desde el gobierno vasco y podría decir que hasta la fecha no hemos contado con su ayuda o que llega usted un poco tarde pero más vale tarde que nunca

quiero creer realmente en su cambio de actitud y le voy a presentar nuestro modelo de desarrollo humano sostenible comenzando por un reto muy inmediato aurrekontuak aipatu dituzu

me dice usted que el presupuesto es la principal herramienta para el desarrollo de las políticas públicas y que es necesario actuar para sacar las medidas adelante bien de acuerdo

doscientos cincuenta millónes de euros adicionales son nuevas medidas presupuestarias puestas encima de la mesa por este gobierno como herramienta para desarrollar las políticas públicas tienen ante sí un test de credibilidad espero y deseo que no le desaprovechen

euskal eredua eraikitzen jarraitzea giza garapen iraunkorraren eredua hain zuzen ere modelo de desarrollo humano sostenible programa de gobierno rendición de cuentas usted habla

poca iniciativa yo le hablo de ciento cincuenta compromisos adoptados de seiscientos cincuenta iniciativas desarrolladas de tareas en marcha y de nuevos proyectos

estos dos últimos años contrato social y rendición de cuentas públicas este es nuestro modelo oso argi izan dugu

gobernar es estrategia es planificación es iniciativa y es evaluación para la mejora continua y primero tenemos claro a dónde queremos ir lo

y no no los retos que usted ha reconvertido en presupuestos que podíamos tener según lo que pudiera ser ya presupuestos que se pudieran dar por parte de otros agentes no otros agentes también hablan

y sin embargo nosotros estamos muy apegados a lo que es la realidad de los datos en función de los retos que nos hemos marcado política de empleo ustedes que presentaron en campaña electoral que su política de empleo eran cuarenta mil empleos públicos

señalar insisto quince objetivos de país el más importante es reducir el paro por debajo del diez por ciento al margen de los vaivenes puntuales la tendencia es positiva y estamos convencido que con el esfuerzo compartido seremos capaces de lograrlo

y usted puede comprobar el grado de cumplimiento de estos quince objetivos de país segundo hemos establecido la estrategia para alcanzar los objetivos hemos aprobado quince planes estratégicos

tercero estamos ejecutando actuaciones concretas en todas y cada una de las áreas del gobierno dice usted que el gobierno tiene poca iniciativa mire le voy a citar solo

este mismo mes de enero pasado agrupación y coordinación de todos los centros tecnológicos y los centro de investigación cooperativos en una alianza vasca que será en europa institucionalización de la mesa de diálogo social proyecto de ley de empleo público aprobado acuerdo de cooperación con la multinacional gestamp que va a desarrollar su centro de excelencia tecnológica en euskadi presentación del nuevo parque de energía solar fotovoltaica en arasur

constitución del órgano rector que gestionará la atención oncológica en euskadi

puesta en marcha de las tres unidades de hospitalización previstas en el hospital de eibar es muy sencillo y se puede resumir en una frase nos dedicamos a gobernar ni más ni menos nos dedicamos a gestionar todos los días

exigencia y eficiencia para dar respuesta a las demandas y necesidades de las y los ciudadanos gobernar para responder a las necesidades y retos de este país

black friday se lo explico luego para no perder tiempo pero no iba por usted precisamente para ser lehendakari el que va primero hay cosas de las que se ha enterado un poquitín tarde si se ha enterado ahora de que a euskal herria bildu le interesa la política económica se ha enterado un poco tarde eh lea la prensa que ya hace tiempo que se está hablando del tema nosotros

porque llega usted un poco tarde a la noticia y sobre la corrección o no de mis indicadores

todos los datos que he dado están actualizados con eustat o con el consejo de relaciones laborales con los informes más recientes por tanto sea preciso

y no a reivindicarlos mejor correr un tupido velo porque por ejemplo

cuando le digo que usted va a lo fácil el reto marcado por la unión europea era alcanzar el tres por ciento de inversión

cien o doscientos o trescientos qué más me da eso no es un indicador realista

marque el porcentaje admitido internacionalmente como referencia del esfuerzo

que así se nos reconoce en europa efectivamente lo somos pero alta innovación es la segunda categoría

para un país que solo puede competir internacionalmente en base a la creación de valor añadido y de la incorporación de tecnología

esto es una cuestión absolutamente clave ustedes y ya lo he dicho en otra ocasión al señor obama le decían que con su verborrea tapaba todas sus carencias y le hacían un chiste y cuando alguien iba a recurrir a donde el le decía tengo un problema no se preocupe tengo un discurso ustedes tienen un manual de gestión de las situaciones lo que va bien gracias a ustedes lo que va mal es culpa de madrid o de eh bildu y lo que podemos tapar con toneladas de propaganda lo tapamos con toneladas de propaganda queriendo hacer un favor a la señora consejera tapia

que el teleberri estaba compuesto de cuatro partes el tiempo los sucesos los deportes y arantxa tapia

porque si este mes sale otra vez ya la tienen que hacer fija miren ustedes con propaganda pueden posicionarse bien en el terreno electoral pero con propaganda no van a tapar los problemas de este país

y había como testigos miembros de su partido la señora betolaza creo recordar en una escuela de baracaldo preguntamos cuántos alumnos

de todos y cada uno de ellos el cinco por ciento segregación segregación en la escuela vasca ya hemos conseguido que los alumnos tengan bajas competencias en tres idiomas tenemos problemas que igualan a todos los sectores al público y al

con el partido popular con los de la plaza de oriente de este sábado o domingo no lo sé con esos quiere usted sacar adelante la educación del país que tiene problemas como estos

nosotros le hemos puesto encima de la mesa y a veces se dice que una cosa es criticar y otra es dar trigo hemos puesto ya sobre la mesa propuestas en este periodo de sesiones para poner en marcha un pacto

programas de atención a los parados de larga duración programas de respuesta a la precariedad juvenil una apuesta por establecer un salario mínimo en esta comunidad de mil doscientos euros

la traslación de los novecientos euros del estado español al nivel de vida que hay aquí son mil doscientos no se limite a constata las imposibilidades o que la legislación no nos deje explore los límites

porque usted da la impresión que también como dice los clásicos clasifica los problemas en dos tipos

solución vivimos en una nueva realidad socioeconómica el mero crecimiento económico no va a generar empleo de calidad

resolver los problemas hace falta un liderazgo y para ese liderazgo y algunos aspectos hace falta liderazgos compartidos y usted tiene a euskal herria bildu dispuesto a determinados acuerdos de país

y deben tener ese revestimiento de acuerdo de país usted no busque a los de la plaza de oriente usted busque a quien está dispuesto incluso siendo

a negociar y a acceder no nos reclame adhesión porque adhesión incondicional no va a obtener pero cuando nos proponga diálogo y acuerdo hablaremos

eskerrik asko legebiltzar buru andrea pues vaya con los acuerdos con los de la plaza de oriente

aquí en el mismo parlamento vasco señor casanova en fin hace usted referencia

del conjunto del país y en esto me baso también para reiterar lo que es su referencia a determinados indicadores con indicadores inexactos

de incremento presupuestario anual comprometido por parte de este gobierno de lo que son los fondos de innovación sí señor casanova con lo que pueda ser la aportación económica

ahora he entendido señor casanova después de su referencia a obama el porqué de la felicitación de ustedes a trump lo he entendido

somos conscientes de las incertidumbres de la economía de su desaceleración a nivel mundial hoy tenemos en los medios de comunicación la preocupación

somos conscientes de esta realidad que nos circunda que nos envuelve estamos ocupados en evitar que esta desaceleración tenga una incidencia negativa en el empleo

personas que no han sido capaces de recuperarse de las heridas de la crisis económica personas que necesitan recibir una renta de inserción

pensionistas que necesitan complementar una pensión insuficiente y no tienen otros ingresos jóvenes que no tienen claro su futuro laboral y tienen barreras para su emancipación

que no han podido sumarse a la recuperación económica al mismo ritmo que las demás lo sabemos somos conscientes y trabajamos todos los días para cubrir estas carencias

planes de choque para la revitalización de zonas desfavorecidas programas de empleo y reactivación económica programas contra la brecha salarial mejoras en la renta de garantía de ingresos complemento a las pensiones más bajas pensión complementaria para los gastos de vivienda nuevas infraestructuras sanitarias y educativas etcétera a esto se dedica el gobierno y desde el principio de realismo

la oportunidad de demostrar con hechos y también desde el principio de realismo

y de los recursos limitados de los que disponemos que también tienen

la vida de muchas de las familias de este país como lo hace el gobierno es su responsabilidad nosotros seguiremos cumpliendo con la nuestra y si en el camino nos encontramos mejor que mejor entre todos para todos eskerrik asko

y que nadie hizo nada para evitarlo y que incluso alguno animaba a este tipo de actos

inequívoco y también lo es nuestro rechazo radical a las actitudes irrespetuosas mostradas en el pasado alarde

baketsuaren balio gorena babesteko es muy evidente que es necesario seguir explorando vías de diálogo para dar pasos firmes hacia el respeto

de la mano del diálogo constructivo y sincero como primer paso para posibilitar vías para el entendimiento es evidente que nos queda muchísimo camino por recorrer pues todavía a día de hoy y esto merece la pena ser destacado es necesario

en hondarribia es necesario que la ertzaintza dicte una resolución para ese día en hondarribia

en males mayores le invito a que en este tema tan complejo y delicado deje de lado la demagogia fácil le invito a que por las vías ya establecidas todas y todos contribuyamos a encontrar un camino de solución

un camino que garantice los derechos de todas las personas y la igualdad eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera

señor lehendakari los hechos objetivos que sustentan la pregunta que hoy le queremos hacer son los siguientes el pasado día quince de enero el señor delegado del gobierno de la comunidad autónoma del país vasco el señor loza exmiembro de esta cámara manifestó con un ejercicio de transparencia que conviene

velocidad fuera una realidad en euskadi en el año dos mil veintitrés ese mismo día

de una manera también muy directa manifestando que este nuevo plazo o este retraso respondería a dos motivos fundamentales

o falta de recursos económicos contemplados en los presupuestos generales del estado ni veinticuatro horas después la señora mendia secretaria general del partido que sustenta su gobierno afirmó también que este es un retraso ya conocido por todos ese mismo día el señor ábalos el señor ministro ábalos en presencia en euskadi volvió a dar una vuelta de tuerca y dijo que no que se mantenía la fecha del dos mil veintitrés la pregunta señor lehendakari es muy concreta qué quilombo es este

y cuál es la fecha que maneja su gobierno para la operatividad efectiva y real del tren de alta velocidad también en la comunidad autónoma vasca muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

eskerrik asko legebiltzar buru anderea señor sémper como usted bien sabe

competencia del gobierno español y en ese sentido siendo que es competencia del gobierno español yo me remito a las declaraciones más recientes del ministro de fomento y
lo que sí puedo asegurar es que las tres capitales estarán conectadas y con las obras hechas en dos mil veintitrés eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

a su afirmación y es que el gobierno vasco tiene una parte de responsabilidad en la gestión de la infraestructura no es menos cierto que sobre esta infraestructura hemos debatido

y no es tampoco menos cierto que afortunadamente llevamos un tiempo sin debatir sobre esta infraestructura en esta cámara sobre todo sin dudar acerca de los plazos establecidos para su culminación y operatividad en euskadi

y una claridad meridiana en cuanto a la operatividad que se concretara en el año dos mil veintitrés

negociando con un gobierno el gobierno del señor sánchez está negociando también unos presupuestos el partido que a usted le sustenta pero sobre lo que usted tiene mucho que decir

veinticinco así pone en los presupuestos generales del estado

solo cabe una interpretación y es que independientemente de las consecuencias que tiene para euskadi

de las consecuencias que tiene para euskadi el retraso del tren de alta velocidad ustedes están empeñados en seguir sosteniendo al desastroso gobierno del señor sánchez desastroso por muchos motivos que seguro que compartimos no lo dirá usted en esta

la realidad es que nuestras capitales están deficientemente conectadas singularmente san sebastián la realidad es que los retrasos sí san singularmente

porque no avalan ni defienden la ampliación de la pista están agonizando infraestructuras como el puerto de pasaia señora tapia en detrimento de otras como el puerto de bilbao y también

a madrid esto es una deficiencia y es un problema para nuestra economía para nuestras empresas y para nuestros ciudadanos y ustedes están avalando

sin duda por un cálculo electoral partidista sin duda

somos el conjunto de los vascos y sí señora tapia singularmente los donostiarras muchas gracias eskerrik asko sémper jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eslabón central del corredor atlántico y forma parte

es evidente que esta infraestructura clave para nuestro país acumula un importante retraso y es evidente que los diferente gobiernos españoles han priorizado otros tramos y otras conexiones

directamente con la red europea usted me habla de las recientes declaraciones de los responsables del gobierno español ya sea el delegado del gobierno aquí en euskadi

de otras personas a las que no creo que haya de asignarle una responsabilidad de gobierno español pero quiero recordarle que en

se inauguró la primera línea de alta velocidad han pasado veintiséis años y durante este tiempo quince años ha gobernado el partido popular y once el partido socialista

mucho más señor sémper mi valoración es que debemos hacer todo lo posible por culminar esta infraestructura lo antes posible

yo me reuní con la comisaria de transportes violeta bulc en bruselas y me sumo a lo que esta ha declarado recientemente la y vasca aportaría beneficios de alto valor añadido a la unión europea

ezarritako epeetan bukatzen laguntzeko el gobierno vasco siempre ha mostrado una actitud constructiva y hemos propuesto fórmulas para acelerar la obra

usted al compromiso del gobierno vasco aun siendo una competencia del gobierno español pues mire de hecho

y gestionados directamente por nuestro gobierno doce se encuentran concluidos y cinco están en marcha el grado de ejecución de lo que corresponde a la responsabilidad asumida en encomienda de gestión por parte del gobierno vasco

según la última planificación aprobada en el año dos mil diecisiete el mayor problema para el cumplimiento de los plazos se encuentra en los accesos a las capitales en donostia actualmente se redacta el proyecto constructivo por parte de eusko trenbide sareak

en bilbao se cerró por todas las administraciones en marzo del pasado año por el gobierno del partido popular

la comisión interinstitucional refrendó el acuerdo el trece de septiembre el acuerdo es completo y nuevamente me remito a las declaraciones más recientes

que dijo textualmente lo que sí puedo asegurar es que las tres capitales estarán conectadas y con las obras hechas en dos mil veintitrés el gobierno vasco

vamos a mantener toda nuestra implicación para que esta infraestructura básica para el futuro de euskadi no sufra más demoras eskerrik asko no será nuestra responsabilidad

insta a la administración del estado a que antes de seis meses

otorgando un lugar destacado a las referidas a centros penitenciarios y a la gestión del régimen económico de la seguridad social

decir verdad igual tampoco le podemos achacar ahora al gobierno de sánchez que no lo haya otorgado un lugar destacado a la seguridad social

es el lugar de la seguridad social fuera del calendario fuera del calendario beharbada

bermeetaz prentsak ateratzen da titular bat eta jartzen du otro pacto con el sello

otro pacto con el sello de urkullu y erkoreka diez años después

erkoreka pretende consolidar el calendario de traspasos aunque cambie el gobierno central ondo oso ondo baina hilabete

el gobierno vasco vincula el éxito del calendario de traspasos a que sánchez apruebe

del cumplimiento del calendario hori da estrategia

que va a seguir el gobierno vasco aprobarle las cuentas al psoe para luego no sé igual pedir el voto para el psoe también en las siguientes elecciones porque si no se va a quedar

el cumplimiento del estatuto es un derecho y un mandato del conjunto de la ciudadanía de la comunidad autónoma del país vasco cuyo cumplimiento no debe estar sujeto

y el blindaje de nuestro autogobierno pues qué es eso lo que está demandando el gobierno vasco

vincularlo a otros acuerdos vincularlo a otros acuerdos y encima sin ninguna garantía inolako bermerik gabe orduan hori da

y si le diéramos ochenta años al gobierno central para el cumplimiento del estatuto

gracias señora presidenta consejeros señora consejera sí nuevamente hablamos de remolacha

interpelábamos sobre el futuro del sector remolachero en álava y en este momento

porque señora consejera desde que en dos mil seis la unión europea plantea la modificación

el sector no sale de la incertidumbre porque la modificación planteada afectó directamente al precio inicialmente de manera que pasó de cuarenta y ocho euros a veintiocho euros la tonelada cuando los costes de producción

y los cuarenta y uno euros hecho esto que distorsionó totalmente la rentabilidad de esta producción ya en esta ocasión

porque la producción y la rentabilidad se vio seriamente afectada según los datos que aporta la diputación foral de álava la campaña

antes de modificar la ocm en álava único territorio del país vasco donde se produce remolacha se sembraron dos mil setecientos sesenta y seis hectáreas con una producción por hectáreas de ochenta y siete toneladas

lo que dio una producción de doscientos treinta mil toneladas y un valor de once millónes doscientos veinticinco mil euros

pero el valor de la producción bajo en cinco millónes de euros

bajada de precio bajada de producción bajada de rentabilidad y es en dos mil quince con la finalización del sistema de cotas aunque se consiguió dos años

y si nos fijamos en la campaña dos mil diecisiete dos mil dieciocho ya terminada la prórroga pues son

hectárea y a pesar de esta producción excelente debido a la bajada de hectáreas sembradas la producción se quedó en ciento cincuenta y ocho mil toneladas y el valor

en esta campaña bueno estamos valorando los datos pero también

hectáreas la campaña ha tenido unas afecciones de climatología y demás que le están reduciendo dicen en un treinta por ciento con lo cual la situación ha ido empeorando señora consejera

hoy estamos pues con esos datos ciento sesenta explotaciones

veinte municipios afectados por estas explotaciones el mayor porcentaje de productores está en el ayuntamiento de vitoria es la zona de mayor calidad y donde más

mínimo de producción para mantener abierta la planta de transformación la planta de miranda que es la que tenemos

se han articulado ayudas de acuerdo con la unión europea de manera muy parecida a lo que se ha venido haciendo en el resto de comunidades autónomas

estabilidad al sector para el periodo dos mil quince dieciséis

sin cuotas que regulan las relaciones recíprocas entre los productores de remolacha y la azucarera de acuerdo con la legislación europea y española

en este acuerdo entre otras cosas se dice que los precios ofertados podrán ser revisados de común acuerdo por las partes si se altera sustancialmente el equilibrio de las prestaciones

adquirido y que la ruptura de este equilibrio puede ser por cambios regulatorios o circunstancias sobrevenidas que afecten seriamente la continuidad de alguna de las fábricas

en cuanto a la oferta de precio para las campañas del dos mil quince

la presente oferta comercial es unitaria e indivisible que tendrá validez para las cinco campañas sucesivas

la realidad es que a pesar de no concurrir las circunstancias excepcionales

de manera unilateral propone una bajada del precio de seis coma cinco euros tonelada lo que supone un recorte del veinte por ciento

justo en esta campaña que como le decía antes la producción se ha visto mermada en un treinta por ciento y señora consejera

hace año y medio y coincido pero es bueno si las partes cumplen si cumplimos con lo firmado pero como le decía azucarera de manera unilateral argumenta a su favor que esta situación

y usted nos decía en aquella interpelación que el sector se tiene que hacer más competitivo

que crezca y además de manera sostenible en el tiempo pero señora consejera no hemos conseguido avanzar estamos

muy vulnerables porque dependemos de una industria que no tiene competencia

a ella y ante esta situación que parece

va a afectar también a la siguiente campaña porque nos encontramos en un escenario de incertidumbre que preocupa a los productores que no saben qué hacer y en muchos casos

igual optan por producir menos o toman otro tipo de producción como alternativa si esto se alarga en el tiempo

difícil de retorno y nosotros lo que le queremos plantear señora consejera es

con diputación foral de álava también con el ministerio porque algo tiene y puede hacer en este caso a qué conclusiones o qué salidas

que hay que buscar iniciativas que puedan dar cierta estabilidad al sector y nosotros hablábamos en la interpelación que le hacía la vez anterior que hay que asentar esa producción

porque donde tenemos el verdadero déficit es en la transformación no solo para este producto pero en este producto especialmente nos hacen muy vulnerables y me parece que eso que nos pasa a nosotros pues parece que también pasa en otras comunidades autónomas yo leía una intervención del señor

porque si no nos quedamos muy débiles nos quedamos en la mitad del proceso

cuál es la propuesta o qué está haciendo el gobierno además de acompañar al sector tenemos

mientras tanto se puede hacer algo además de esperar al arbitraje que como le digo

el inicio de la nueva campaña y la producción nada más

decía la señora lópez de ocariz que la remolacha azucarera

y que ocupa las hectáreas que nos decía en este momento en álava y una actividad relacionada con bastantes explotaciones ciento treinta y cinco concretamente en álava

de álava esta remolacha además se transforma para conseguir azúcar

y toda ella se lleva a la empresa azucarera sa que es una empresa que actualmente depende de la

es la de miranda a la que todos los productores de álava llevan su producción

acuerdo interprofesional que se firmó en el año dos mil quince y que definía dos periodos de actuación tal como usted decía

asociada a lo que era la cuota de producción y a partir de ahí albergaba otro tipo de actuaciones teniendo en cuenta además que en el año dos mil diecisiete se

siembran mucho más y se ponen a producir unas cantidades de remolacha azucarera a precios

los actualmente existentes por ejemplo en el territorio de álava básicamente porque sus condiciones agroclimáticas son diferentes a las nuestras y en este caso más beneficiosas para la puesta en producción de este tipo de cultivo pluviométricamente son mejores y hace que la producción

eso supone que se haya producido una sobreproducción de remolacha azucarera y por tanto de azúcar en europa

a una diferencia de precios que se están abonando en estos momentos

del mercado también unos datos en europa antes se producían trece millónes y medio de toneladas de azúcar francia todos ellos producía alrededor de tres millónes

y actualmente se han multiplicado estos números de tal manera que la producción es estos momentos es realmente relevante se estaban abonando o se están abonando en el año dos mil diecisiete bueno estamos en mínimos históricos trescientos veinte

antes del año dos mil diecisiete la reducción por tanto es tal y como usted decía más del treinta y seis por ciento

tras la producción lo que ha costado después la puesta en marcha

además la campaña de dos mil dieciocho ha sido realmente crítica la peor de los últimos veinte años vamos a decir en cuanto a producción por hectárea

la principal razón además ha sido precisamente la climática la existencia de una humedad excesiva lo que ha conducido

cercospora que lo que ha hecho es proliferar una situación que ya se venía produciendo en otros años pero este año de una forma muchísimo más relevante y así como ha atacado al pino radiata del cual hablaremos posteriormente también en este caso a la producción de la remolacha azucarera por tanto

de forma unilateral tal como usted decía se decidió por parte de azucarera bajar el precio de la tonelada de remolacha de treinta y dos coma cinco euros

veintiséis euros a pesar de que últimamente en las últimas fruto de la negociación emprendida con azucarera de forma directa estos veintiséis euros han sido elevados un poco y esperamos que además se consiga elevar más estos seis coma cinco euros de reducción del precio de la tonelada de la remolacha desde luego incumplen claramente el acuerdo

nos preocupa de forma relevante y estamos hablando por una parte y negociando con la propia azucarera pero también hablando con las administraciones que están concernidas exactamente igual que nosotros con castilla león y también con rioja

y se han producido unas cuantas reuniones y conversaciones a todos los niveles reuniones concretas trece de diciembre quince de enero y en este momento también estamos de forma directa hablando con el consejero delegado y

agrícola de lo que es la empresa azucarera con el objetivo de conseguir elevar ese precio de los veintiséis euros y que se trate de cumplir lo que se había firmado las diferentes partes implicadas desde luego y en constante colaboración por supuesto con la diputación foral de álava como no puede ser de otra manera

ha sido menor como consecuencia de la climatología el compromiso por parte de las administraciones es máximo y

tenemos diferentes medidas puestas en marcha para la ayuda a lo que es la producción como usted bien sabe

a lo que ocurre en la comunidad de la rioja o en la comunidad de castilla león limítrofes y que están sufriendo el mismo problema que nosotros puesto que las ayudas puestas en marcha como ustedes sin duda conocen tienen que ejecutarse durante cinco años perdón el acuerdo es para cinco años y tienen que ejecutarse al menos cuatro años para ellos el cuarto año era dos mil dieciocho para nosotros es el tercer año por tanto

continuar con esas ayudas porque si no los agricultores se verían obligados a devolverlas por tanto tanto las ayudas de feader como las puestas en marcha por la diputación deberían

pero si nos vamos concretamente a parte de las ayudas que usted conoce sin duda y que no voy a repetir en este momento cuáles son las actuaciones que hemos emprendido y que estamos llevando a cabo de forma directa bueno por una parte y como un acuerdo con la diputación foral de álava

junto con el resto de comunidades autónomas y el ministerio de agricultura de ese acuerdo que estaba firmado en el año dos mil quince y

se consiga ese cumplimiento es una medida que desde luego no podíamos dejar pasar porque es muy relevante además de eso exigimos

instalaciones de azucarera en miranda porque consideramos que

tiene que ser relevante precisamente por esa circunstancia que le estaba comentando seguimos y trabajamos en las negociaciones directas con

garanticen la estabilidad del sector y nos permitan que parte

defender un poco las ayudas acopladas para el sector

manteniendo los máximos niveles de ayuda porque si no vamos a transformar ese tipo de agricultura

que no se puede realizar de un día para otro que lleva un tiempo y además perderíamos esa producción de remolacha azucarera y quizá podríamos introducir una sobreproducción en otro tipo de producción agraria y además nos llevaría casi a hacer un monocultivo en cualquiera de las otras circunstancias cosa que

de este impacto que podría tener hipotéticamente la liberalización del sector desde

poder modificar el cultivo de remolacha azucarera a remolacha de alimentación que requiere una modificación algo menor de tal manera que diversificáramos un poco el sector

a otro tipo de alimentación ese estudio se ha entregado en noviembre de dos mil dieciocho lo estamos analizando con la propia diputación foral de álava ponerlo en manos del propio sector y tratar de implementar medidas que nos permitan insisto diversificar el cultivo pero además diversificar el sector de transformación y esas son las medidas más directas en las que estamos trabajando pero de inmediato lo que tenemos que hacer es intentar además del arbitraje conseguir un acuerdo más beneficioso y si desde luego fuera posible ese es nuestro objetivo que se cumpla de forma eficaz el acuerdo firmado en el año dos mil quince

pero es un tema de medio largo plazo que tenemos que trabajar tanto con la diputación como con el resto

sí gracias señora consejera efectivamente estamos ante un sector muy importante por muchas

de vista económico un sector al que lo hemos estructurado con mucho apoyo administrativo que se ha dedicado muchos recursos a dejarlo en una situación

altamente cualificada y que durante unos años ha funcionado maravillosamente pero que

el mercado y eso está teniendo unas consecuencias importantes y de muy largo tiempo con lo cual esto genera

como le decía antes una baja motivación para que

haya alternativas y luego los efectos que todos conocemos tanto sociales como culturales en el ámbito rural que eso al mantenimiento de la población o a frenar el despoblamiento que hay en este momento por lo tanto efectivamente tiene muchos factores por los que merece la pena trabajar por él yo esta semana el día cuatro leía un artículo que sacó azucarera

que ellos están en pleno derecho de la decisión que han tomado pero que además la reducción del stock mundial y la producción especialmente en europa anticipan ya

que azucarera asume el compromiso de pagar el complemente en cuanto se recupere el precio del azúcar sí

y está en angustia y yo creo que nosotros además de trabajar por esas medidas que aprobamos en esta cámara hace año y medio que sé que están trabajando en unos ámbitos tenemos que hacer algo para generar confianza en el productor y que

siga apostando por producir esto porque es cuando se cae esta producción

y eso pasa en esta producción especialmente y cuando buscan la alternativa de otro producto que no les genera esta incertidumbre

sigan en ello nosotros aprobamos en esta cámara como le decía

que ustedes gobierno vasco la diputación foral de álava las comunidades de regantes las

de productores debían de trabajar por adoptar medidas agronómicas técnicas de innovación marcos contractuales que posibiliten el incremento del cultivo y eso

la verdad que efectivamente la climatología y otras circunstancias

en cómo frenamos atacar determinadas enfermedades con otros métodos y otros medios porque es que o aprendemos a eso o si no no vamos a poder cultivar

estancados con tendencia a la baja en volumen de producción un sector como le decía desmotivado en esta casi permanente situación de incertidumbre y esto como le decía hace peligrar la permanencia de la estructura industrial y

muchos productos pero no transformamos con lo cual nos quedamos con la parte más compleja la más costosa la que más gasto medioambiental y efectos tiene y la transformación se nos va

no lo captamos y creo que tenemos que investigar hacer muchísimos empeños para atraer sistemas de transformación a este producto que no de un valor añadido porque si no

este sector especialmente va a poder sobrevivir a la situación que está teniendo vamos

tremendo y por lo tanto hay que buscar alternativas alternativas para el azúcar alternativa de producción sí

pero también alternativas al azúcar y yo creo que en esos sí que tenemos herramientas para poder trabajar y

a este entorno para que sea asequible y que pueda contribuir que también puedan compartir los productores

si no nos vemos a ver en una situación muy complicada nada más muchas gracias eskerrik asko

señora lópez de ocariz efectivamente yo creo que

más ayudas de las que ya están planteadas porque existen también planteamientos en otras comunidades y por parte de algunos miembros de algunas asociaciones

la posibilidad de poner en marcha algunas ayudas de tipo minimis pero entendemos que ese concepto no es asumible por nuestra parte porque

no son los que cultivan la remolacha si no la propia azucarera por tanto tenemos que emprender otro tipo de actuaciones necesitamos tal como usted decía y comparto plenamente

de tener por una parte una diversidad de cultivo

dentro de ese estudio que se ha puesto en marcha tal como le decía y que ha sido entregado recientemente sí hay dos tipos de actuaciones una de ellas es además del azúcar qué otro tipo de elementos qué otro tipo de

puedan utilizar toda la producción de álava y además intentar diversificar un poco el cultivo que nos lleve a otro tipo de alimentos que quizá además tengan otro tipo de beneficios y sean bien asumidos por los usuarios por los que en este momento vamos a adquirir todos esos alimentos

tenemos sobreproducción en europa lo estábamos viendo tenemos algunas dificultades de producción tal como usted decía y tenemos que además hacer frente a esas dificultades que hacen que la producción aquí sea más costosa

hacer frente a determinadas plagas que se nos producen y por otra parte no hay que

el azúcar precisamente lo que estamos haciendo es tratar de conseguir una alimentación más baja en azúcar lo que nos lleva a pensar que la producción

luego si no somos capaces de diversificar ese cultivo llevarlo a otros elementos que sean más fácilmente asumibles por los consumidores y además estoy de acuerdo en buscar atraer algún tipo de industria trasformadora pues no parece que vayamos a tener un futuro muy desde ese punto de vista una vez definida esa estrategia y acordada con el sector no descartamos no estamos también trabajando a través de

también con el sector en el primer sector tanto con hazi como con asti tratar de buscar

que con capital también local pueda desarrollar alguna actividad

tenemos nadie que podamos decir estamos trabajando ya con una idea muy concreta pero sí nos gustaría poder también abordar esa segunda parte en este momento creo que lo que nos toca es

diversificación y además transformación en eso estoy totalmente de acuerdo con usted mila esker eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamabigarren

los tratamientos realizados en nueva zelanda únicamente contra la banda roja

en ellos se afirma que el tratamiento es razonable eficaz en las circunstancias ecológicas y climáticas de ese país

en euskadi llevamos tiempo trabajando en lo que es la prevención y el hacer frente a diferentes enfermedades que afectan a nuestros bosques y en este caso también a la banda roja y a la banda marrón que nos ha afectado de una forma excepcional debido a la climatología del pasado

afectando el seguimiento que estamos realizando a nuestros bosques además no lo hacemos solos no lo hace solo el gobierno junto con neiker

que son realmente las competentes en la gestión de esos bosques y en el análisis y el ataque de forma directa a lo que está ocurriendo se hacen análisis de diferentes tipos en cuanto a origen de enfermedades en cuanto a disponer de datos epidemiológicos de qué es lo que está ocurriendo y de la forma más eficaz

de las enfermedades que puedan estar ocurriendo además de analizar como usted decía planificar de alguna forma hacer lo que se ha planificado medir lo que se ha

continuar mejorando que es el ciclo virtuoso en el que nos tenemos que mover

de investigación pero uno concreto dirigido a esta enfermedad

nos estamos dedicando concretamente desde neiker

en este programa específico para esta enfermedad lo que se está haciendo es estudiar la epidemiología concreta de esta enfermedad el de la banda roja y de la banda marrón

que hacen agravar o mejorar la situación de la misma en cuanto a temperatura el momento de desarrollo de los hongos la producción la localización el origen y demás

labores muy muy detalladas en cada uno de los ámbitos de los diferentes bosques en qué lugares es más agresivo en qué lugares menos por qué afecta más a unas zonas y por qué afecta

investigamos además como tercera línea posibles estrategias de manejo que incluyen una evaluación de sustancias de efecto curativo o preventivo de la enfermedad

con otro tipo de estrategias y de sustancias que nos permitan evaluar qué es lo que está ocurriendo usted decía que hay datos probados en nueva zelanda es cierto hay datos probados en chile también

pero también desde neiker se han hecho junto con las diputaciones y especialmente la de bizkaia en este caso un análisis concreto de la utilización de ese óxido para el cual tenemos autorización porque lo que estamos haciendo es investigar y se ha observado que

aquí en euskadi a nivel de investigación directamente sobre el pino

localizar y reproducir material menos sensible a la enfermedad porque si se

en algunos de los bosques que tenemos hay zonas o incluso algunos árboles algunos pinos que están rodeados absolutamente

o por pinos afectados por banda marrón y banda roja que sin embargo se mantienen perfectamente sanos y eso significa que hay alguna variable que los hace mantenerse sanos queremos analizar o estamos analizando por qué esos sanos en la mitad de una zona perfectamente afectada

en concreto de esta forma tendríamos variedades que son resistentes por alguna razón especial a la afección de la zona de la banda marrón y la banda roja

ayudar a mejorar esos tratamientos que estamos llevando a cabo de forma experimental y el centro for genomic regulation de barcelona también está realizando una secuenciación

y el porqué de esa agresividad que tiene la colonia que nos está afectando en euskadi en un momento concreto si existe una razón genómica o no se ha establecido además una red de trampas por esporas para seguir la evolución de la enfermedad más cosas se están tratando no solamente el oxido cuproso le decía hasta setenta sustancias diferentes en ese tratamiento experimental que estamos y analizamos no solamente la afección sobre el pino de tal manera que pueda tener o no efectos curativos sino que analizamos todo el impacto ambiental que puede tener

posibles acuíferos si existieran en las cercanías y sobre todos los elementos vivientes que puedan existir en los ámbitos

como afecta a la enfermedad y además como afecta al medio ambiente insisto setenta diferentes sustancias y además línea de investigación abierta sobre bacterias presentes en las raíces de pinos sanos y que no han llegado a afectar a esos pinos y que están rodeados de pinos que están enfermos pero que aun afectando a las raíces no consiguen llegar

bueno se está haciendo una evolución de la enfermedad de forma geográfica además muy detallada que nos permita constatar el avance en función de

permita analizar si ese efecto de humedades de temperaturas tiene una consideración especial en la situación en la que nos encontramos

en invernadero de material proveniente de algunos otros lugares estamos también utilizando pino radiata proveniente de chile y proveniente de nueva zelanda que han

a la enfermedad en sus correspondientes lugares para ver si los podemos utilizar aquí y llevamos ya un tiempo haciendo ese tratamiento desde neiker pero no solamente estamos tratando sobre

diferentes tipos del género pinus que podrían ser sustitutivos al pino radiata que tenemos en este momento en euskadi en definitiva las administraciones no solamente estamos pensando en atacar de forma inmediata la enfermedad que nos permita parar la situación que tenemos sino que es una

tener unos bosques sanos en el futuro y por el momento esto es

respuesta del departamento de medio ambiente se nos trasladó verbalmente que el plan de aplicación correspondía realizarlo a las diputaciones forales y que aún está en elaboración azaroan izan zen hau

ingurumen sailak erantzun ziguten por lo que este departamento no dispone en estos momentos de información detallada respecto al eventual plan de aplicación

se pueden destacar por su interés en lo relativo a la materia de aguas estudios acerca de la evaluación del impacto ambiental de los fungicidas del cobre y sobre niveles de cobre en los cauces tras aplicaciones aéreas de esta sustancia que se citan en el apartado introductorio del presente informe

además sí tengo que decirle que hay datos científicos que avalan la capacidad que tiene el óxido cuproso para detener la enfermedad de la banda y que la agencia europea de protección de plantas recoge que los tratamiento de cobre son

lo acoge o lo recoge la agencia europea y lo que estamos diciendo es que

una forma de tratamiento un tanto excepcional también en este caso y así lo recoge la normativa que en situaciones excepcionales se pueden autorizar medidas excepcionales no obstante nuestra intención es continuar con la investigación que se está realizando de una forma rigurosa y analizando el tratamiento tanto en vía aérea de una forma experimental que para eso tenemos autorización como por vía terrestre y analizar la diferencia que se puede producir en el impacto sobre la propia enfermedad en el pino como sobre el medio ambiente y todo el entorno de esa producción pero tenemos que ser conscientes

por la autoridad de seguridad alimentaria europea la efsa que en diciembre de dos mil diecisiete emite un dictamen sobre el cobre que no ha modificado su autorización

utilizar en esta situación excepcional insisto algo que está avalado por la propia y que tiene los informes suficientes a nivel de unión europea

nada especialmente dañino somos cuidadosos y queremos ser cuidadosos pero vamos a seguir tratando de parar la enfermedad a corto plazo y analizar la posibilidad de su parada y su alternativa a

en diciembre monocultivo en euskadi no menos

a partir de ese momento se impulsan todas las actuaciones administrativas previstas en la legislación de contratos administrativos que como es sabido suponen como hitos más importantes la publicación del anuncio de licitación de obra en junio de dos mil diecisiete

y el acta de comprobación de replanteo que fue el nueve de marzo de dos mil dieciocho todas estas actuaciones tienen un marcado carácter técnico

comienza propiamente la ejecución de las obras ahora

tal y como nos comprometimos y los niños y niñas de errekabarri podrán disfrutar de un nuevo colegio

estamos a tiempo de hacer posible todavía que se cumpla el compromiso

que se adquirió por parte de su departamento hace un año tanto a la asociación de padres como a la dirección como estando presentes la asociación de vecinos si eso no es así

por diferentes instancias que ese compromiso se adquirió si no se adquirió que se aclare

estamos a tiempo de que se pueda cumplir ese compromiso que creo que sería favorable para todo el mundo es absolutamente necesario en el barrio creo que sería bueno para el propio departamento también sin ninguna duda es lo ideal para el centro iniciarlo ya en las nuevas instalaciones tener hecho el traslado en el verano poder utilizar desde el principio teniendo en cuenta además el alto grado de matriculación la necesidad de nuevas estancias cómo está en estos momentos también

la cuestión es que se necesita es urgente y estamos a tiempo para hacerlo volvemos a decirles qué va a hacer porque esa es la pregunta y esa es la clave su departamento para cumplir ese acuerdo ese

creemos si no es así que se aclare y desde luego que es absolutamente necesario es muy simple tenemos tiempo tenemos meses se pueden acelerar las obras

obstáculos insalvables para que eso se pueda hacer son muchos años de traslados son seis años de tener que movilizarse son muchos minutos cada día

a partir del acta de replanteo nueve de marzo de dos mil dieciocho haga las cuentas debemos ser realistas y reconocer que en todo proceso contractual y más aún en la ejecución de obras

puesto que existen aspectos que se van dilucidando a lo largo de la obra así por ejemplo aunque se han mantenido reuniones con el ampa y dirección del centro y se compartió con ellos el proyecto ejecución

con posterioridad han solicitado y se han aceptado cambios como la modificación de la disposición de los patios y el aumento de zonas verdes

por tanto la opinión del departamento entendida esta en la acepción de valoración y análisis de una realidad concreta no puede llevarse a cabo como no puede ser de otra manera hasta que concluya el proceso

hasta ahora han escuchado las noticias ahora les contaremos la verdad

el reglamento de matriculación y ahora vamos a ver cuál ha sido la realidad como sabrá el veinticinco de enero

tan solo tres días de iniciarse la campaña de matriculación la delegación de educación del gobierno vasco en araba rectificaba y finalmente aceptaba pretensiones de varios centros concertados de la ciudad de gasteiz sobre el proceso de prematriculación un cambio de última hora que ha permitido que algunos colegios concertados la mayoría

se opina que se trata de un criterio discriminatorio y cuatro días después deja de serlo qué ha pasado porque a mí algo se me escapa qué ha pasado o qué ha cambiado en esos cuatro días

en el último minuto el último día en el que se iba a publicar cómo

con este cambio de última hora señora consejera volvemos a decirlo lo que este departamento sigue perpetuando es una desigualdad social creciente en la ciudad de gasteiz y además no lo digo yo hay un informe de esta misma semana del ayuntamiento de gasteiz que vuelve a decir

una euskadi cohesionada pero después unas semanas después tenemos

educativo y la brecha es económica la brecha que tenemos y además en gasteiz aún más y vuelvo a decir el informe el ayuntamiento de gasteiz está encima de la mesa

cada vez aumenta y cada vez con estas decisiones cada vez aumenta más eskerrik asko martínez zatón uriarte

como ya le he indicado los criterios generales de baremación recogidos en el decreto que abarcan desde la asistencia de hermanos y hermanas en el centro progenitores que trabajan en el centro

son los mismos para todos los centros y solicitudes y sobre ellos recae principalmente el peso de la baremación y del resultado de la misma además

esta tiene carácter voluntario y sus límites se establecen en la propia normativa y son públicos esta puntuación está presente tanto en centros públicos como concertados

del consejo escolar de estos sesenta y ocho cuarenta son públicos y veintiocho concertados y en relación a la posibilidad de valorar la elección del centro en primera opción sepa que son seis centro públicos y ocho concertados los que han otorgado un punto

dicha medida ha sido aceptada al igual que otros criterios propuestos al no tratarse de ninguna forma de un elemento discriminatorio repito tanto en centros públicos como concertados

en todo caso tal y como venimos realizando en ejercicios anteriores al finalizar el proceso analizaremos todas las variables y evaluaremos el impacto de las nuevas medidas incorporadas para este curso

andrea sailburuok osasun sailburua el informe de la institución

dos mil diecisiete se puede decir que corroboran estas irregularidades y aparte pone claramente en cuestión que se hayan garantizado los principios de igualdad mérito y capacidad

e imparcialidad en todo el proceso el informe vuelve a poner el foco en la elección de los famosos expertos que han elaborado los exámenes

que además algunos son miembros de los tribunales y además el resto de los miembros del tribunal desconocía esta circunstancia

quién ha designado a las personas que han elaborado los exámenes he tenido oportunidad

la valoración que usted ha realizado sobre este informe en la primera pregunta en relación al contenido del informe que la considera positiva pero también le quiero preguntar señor consejero sobre una valoración concreta y exacta sobre esta cuestión en la que hay sí se hace hincapié sobre el informe del ararteko en relación a que la cuestión fundamental estriba

el informe en relación a las conclusiones que realiza en relación a este aspecto concreto eskerrik asko garrido

tal y como el mismo día en que se hizo público el informe del ararteko ya señalamos y en la línea de lo que hemos respondido en esta cámara esta mañana

agradecemos las recomendaciones del ararteko y valoramos positivamente el informe como usted misma ha señalado en su pregunta

un análisis de la gestión operativa de los procesos selectivos a partir de los resultados no previamente fundamentalmente el informe si ha tenido usted la oportunidad de leerlo verá cómo analiza

a partir de la realización de las pruebas selectivas y justifica el por qué no ha entrado en lo anterior

y remarca enfáticamente la total colaboración y transparencia ofrecida tanto por el

en todo el proceso el informe en ningún momento cuestiona ni las bases generales ni las bases específicas de la ope bi mila hamasei es más reconoce que los acuerdos sindicales

del dos mil diecisiete son los que han definido la configuración organizativa

para esclarecer y culminar la ope con garantías valora positivamente los informes psicométricos

es de gran valor e interés y en lo que se refiere a las decisiones adoptadas por la dirección de recursos humanos de osakidetza señora garrido el informe

y le leo textualmente que han sido decisiones razonadas y motivadas y se encuentran documentadas beraz esan dudanez positibotzat hartzen dugu

pero aparte de valorar positivamente el informe yo le he hecho una valoración concreta de una cuestión que me parece que el informe además hace hincapié y además usted sabe

a la elaboración de las pruebas selectivas que una de las recomendaciones además señala expresamente que deberían de hacerse por el propio tribunal y a día de hoy señor consejero yo esta pregunta

en numerosas ocasiones en las sucesivas comparecencias parlamentarias en esta tribuna seguimos sin tener la respuesta a quién

de proporcionar la lista de las personas que elaboran los exámenes creo que esto no es una cuestión baladí señor consejero creo que es crucial saber quién proporciona esa lista de los exámenes qué personas elaboraron los exámenes como le digo cuestión que queda sin respuesta

creo que esta cuestión al igual que otras cuestiones todavía están sin aclarar esta es una cuestión fundamental porque cuando hay sospechas de filtraciones sabemos que ahora toda esta cuestión está siendo analizada por los tribunales y se están produciendo investigaciones por parte de la fiscalía y actuaciones concretas cuando

de exámenes absolutamente fundadas y con unos resultados que además

que ha habido esas sospechas pues esta es una pregunta

responder al igual que otras preguntas creo que no se ha respetado por parte de osakidetza la dirección de osakidetza debidamente también el papel de los tribunales y en ese sentido

sobre la mesa y hemos denunciado la tutela que se ha ejercido también sobre los tribunales pues que se le recomienda que se repitan los exámenes

si las irregularidades no eran tan importantes o inexistentes por qué se repiten algunos exámenes por qué unos sí y otros no

la motivación de la apertura de algunos expedientes informativos es decir demasiadas cuestiones controvertidas señor consejero todavía encima de la mesa y es lo que pretendíamos a través de esta pregunta que usted nos valorara al margen de decirnos que valora positivamente el contenido del informe del ararteko cosa que nosotros compartimos y a la vez también

orain arte bezala señora garrido yo creo que usted conoce las preguntas que ha hecho porque

independientemente de que al parlamento se le ha facilitado toda la información

y han podido consultar ustedes toda la documentación tanto de los informes psicométricos como de los expedientes como lo que se ha planteado aquí en las comisiones como las conversaciones que personas

y yo mismo he tenido con usted luego me está preguntando usted algo que ya sabe

refleja claramente que la dirección de recursos humanos es la que tiene la responsabilidad de relacionarse con el ivap

quien define las personas que colocan los primeros exámenes

aspectos controvertidos entre diferentes partes del propio informe del ararteko en cualquier caso el informe del ararteko

irregularidad y el ararteko lo deja claro desde la introducción y refleja claramente que se ha sido absolutamente transparente con el ararteko tanto desde el ivap

relativas a las pruebas de anestesiología cardiología y angiología que obligaban a la repetición de los exámenes tal y como hemos venido denunciando y también explica el informe del ararteko fue la dirección de recursos humanos de osakidetza tras elaborar los informes correspondientes

determinadas decisiones para a continuación tras darles la oportunidad de pronunciarse

última de resolver sobre la repetición de las pruebas elkarrekin podemos en comisión del veinticuatro de octubre puso en duda al igual que lo hace el ararteko en su informe

elaboró para la repetición de unas pruebas y no de otras una decisión totalmente arbitraria tomada con celeridad para tapar rápidamente el escándalo y sin una investigación seria ante la repetición de las pruebas de anestesia angiología y cardiología elkarrekin podemos defendió de remodelar los tribunales de estas especialidades para poder repetir los exámenes con todas las garantías al igual que el ararteko mediante su recomendación

y usted y los grupos que sustentan al gobierno pnv y pse han negado una y otra vez esta posibilidad

que permitiera dicha remoción de miembros del tribunal de su puesto han insistido en la autonomía funcional de los tribunales para justificar las repeticiones

quien tomó la decisión ahora que ararteko en su informe posibilita y recomienda además la renovación de los tribunales cuyas pruebas han de repetirse y lo hace basándose además en pronunciamientos del tribunal supremo existencia de velar por la imparcialidad del proceso selectivo hace que se entienda necesaria la renovación de la composición del tribunal calificador y opina que osakidetza debía haberse planteado el nombramiento tribunales como único modo de asegurar la imparcialidad objetiva preservando en todo caso la presunción de inocencia de los miembros de dichos tribunales

nos enterábamos por la prensa que aceptaba y compartía de muy buen grado las recomendaciones que ha realizado el ararteko en torno a la ope de osakidetza tras las irregularidades detectadas en algunas pruebas

y aseguraba que las incorporaría en el futuro lo ha vuelto a repetir hoy en esta cámara y sin ápice de autocrítica por cierto

van a trabajar en medidas de mejora van a culminar la actual ope con todas las garantías

porque lo que se trata es de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público y usted no las garantizó y me quedan dudas de si tiene voluntad de hacerlo ahora tal y como menciona el ararteko en su informe la sospecha de filtración a dado lugar a una importante alarma y desconfianza social alarma generada por los fraudes de las ope dopadas de osakidetza y engordada por su mala gestión

han trabajado por esconder el escándalo y ahora trabajan por esconderle a usted por eso le hago la siguiente pregunta

la recomendación número doce del ararteko que dice que proceda a la renovación de la composición de los tribunales en el eventual escenario de repetición sí o no

macazaga andrea le voy a leer lo que usted no ha leído la recomendación número doce que recoge el ararteko es su informe señala textualmente que ante un eventual escenario de repetición de pruebas bajo sospecha de filtración se proceda a la renovación de la composición de los tribunales que ante un eventual escenario de repetición de pruebas bajo sospecha de filtración

es una decisión en tres tribunales que está condicionado por la existencia de varios recursos en el contencioso administrativo y por el momento los jueces no han tomado una decisión

respecto a la suspensión cautelar de repetición de pruebas han sido de diferente signo concretamente una

denegada lo que viene a confirmar la complejidad de las decisiones a adoptar

le repito lo que ya hemos señalado tanto al propio ararteko por escrito como hoy en esta cámara después de analizar el informe valoramos positivamente su contenido todas las recomendaciones y una vez realizado el pertinente análisis jurídico nos comprometemos a incluir sus aportaciones en la propuesta

y tomar esta cuestión como bandera esa no es la recomendación que ha realizado el ararteko se lo vuelvo a recordar la decisión de repetición o no de las cinco pruebas

es fácil de entender que las decisiones de la administración pública en este caso de un ente público dependiente del gobierno sobre los tribunales o sobre otras cuestiones se deben adoptar atendiendo a las recomendaciones de sus servicios jurídicos entenderá también que a expensas de una decisión judicial no parece lo más adecuado tomar decisiones

no se preocupe por tanto porque tomaremos las decisiones oportunas cuando haya que tomarlas y lo haremos con todas las garantías jurídicas le guste a usted

que le recuerde la recomendación número tres del ararteko que también asumimos que todos los agentes invita a todos los agentes implicados

un especial compromiso para no renunciar a la incorporación de nuevas mejoras e innovaciones

que parece que usted obvia elkarrekin podemos es el único grupo el único grupo de esta cámara que ha desestimado expresamente y además por escrito participar en el trabajo que el departamento de salud y osakidetza han organizado para presentar ante parlamento un nuevo modelo de ope está visto ha declinado participar porque acepta las recomendaciones cuando le gustan y no cuando no le gustan se lo voy a volver a repetir el departamento de sanidad

las doce recomendaciones y seguiremos el criterio del ararteko

tardes ya a todos señor consejero hoy la verdad es que la interpelación que le hago las preguntas que le hago

hemos tenido en otras ocasiones porque creo que dependiendo de que sea lo que me conteste incluso es para propio lucimiento del gobierno y de las instituciones implicadas en esta interpelación porque presentamos una iniciativa relacionada con san mamés con un campo del que tenemos que estar orgullosos todos los vizcaínos y todos los vascos una interpelación que en su caso pudiera o no derivar en una

exclusivamente desde el punto de vista deportivo o desde el punto de vista del interés general

pudiera apoyarla le preguntamos hoy sobre la posibilidad de que san mamés sea la sede de una

de clubes y como le decía es evidente que no tiene esta iniciativa ninguna connotación política sino exclusivamente de carácter deportivo y económico y

cuando se han celebrado eventos deportivos internacionales en bilbao en el país vasco los beneficios económicos han sido bien claros y por no aburrirle le voy a poner dos ejemplos las finales europeas de rugby que tuvieron lugar en bilbao tuvieron un impacto económico directo en euskadi

de euros y aunque no se cumplieron todas las expectativas que en su momento se generaron aun así

económico directo fue de veintiocho millónes frente a una inversión inicial

del total de los ochenta y cuatro mil espectadores que acudieron a bilbao

quinientos asistentes procedían de fuera de euskadi eran originarios de cincuenta países las finales fueron vistas por ciento quince países del mundo

con un gasto medio de ciento cincuenta y tres euros y siendo el gasto medio

y de los que vinieron el ochenta por ciento señalaron que tenían intención de volver a visitar

manifestó que recomendaría euskadi como destino turístico y con relación a la población

enormemente positivo si ponemos otro evento deportivo por ejemplo la vuelta

en torno a un millón y medio de personas únicamente en españa y fue emitido a ciento noventa países con cuatrocientos millónes de espectadores solo en la noche

beneficios por lo tanto señor consejero está claro los beneficios económicos de publicidad de imagen

a euskadi supone este tipo de eventos no solamente porque bizkaia y bilbao forma parte de euskadi sino porque euskadi es un país muy pequeño y es un país en el que si uno viene a visitar bilbao

va a otras partes de euskadi y si con el rugby si con

el futbol tiene una dimensión innegablemente mucho mayor el gobierno vasco forma parte

por lo tanto este gobierno tiene posibilidad de conocer y de impulsar de saber cómo va en su caso la celebración de una

tres competiciones fundamentales es verdad que la joya de la corona la que más traería sería la final de la champions nosotros se lo digo sinceramente y

dijese exactamente cuáles son los requisitos porque más allá de los que podemos conocer por medios de comunicación

se habla extraoficialmente de los aforos pero no sabemos exactamente si es una norma escrita el aforo de más de setenta mil

acogerla pero en todo caso no es la única competición la final de la champions existe también otra competición que es la europa

y es un evento también de primer nivel que se ajusta perfectamente a las dimensiones de la ciudad y a las dimensiones del campo y por último existe una tercera también final europea la supercopa de europa que es la que enfrenta a los dos ganadores de la champions y de la europa league que aunque tradicionalmente se venía celebrando en mónaco sin embargo a partir de que ha salido de ese estadio se ha celebrado en otros

ha sido infinitamente mayor con lo cual también sería una buena competición en cualquier caso estamos hablando de competiciones de primer nivel cuyo impacto económico directo e indirecto aunque es difícil

e intangible sin embargo creemos que estarán todos de acuerdo que es ingente estamos hablando no solamente como digo del impacto económico que produciría en bilbao en bizkaia en euskadi sino

que se daría de euskadi que ese evento

de países y por lo tanto es un valor seguro sobre todo cuando estamos hablando del futbol porque

lo sabemos que el futbol mueve a miles y miles de ciudadanos y si se organiza bien el éxito está más que garantizado y yo creo que en bilbao en bizkaia

un reto evidentemente desde el punto de vista organizativo un reto para nuestros servicios hoteleros un reto para nuestros restaurantes pero creo que nosotros seríamos capaces a ese reto sería también un reto desde el punto de vista de la seguridad

que desde el punto de vista de la seguridad estamos a la altura como lo estamos en los medios de transporte con lo cual creo que no nos falta ninguna de las circunstancias necesarias para organizarlo estamos ante una oportunidad porque ello supondría un escaparate

inmejorable además

que saque pecho de san mamés creo que es de los campos en euskadi el que mejor

como un estadio de categoría cuatro la máxima calificación que se le da

y tenemos además una ciudad bilbao también digna de mostrar con lo cual tenemos todos los ingredientes para organizar y tener éxito en un evento de estas características qué es lo que hace falta el impulso

se planteó se ha planteado ya en otra institución se nos ha venido a decir que llegábamos tarde es decir que esto ya

se tiene pensado realizar que eso sí que es cierto que apareció en algún medio de comunicación y que ya se habían dado los trámites oportunos permítame que le diga que normalmente

se organiza algo o se tiene ya decidido o se han dado pasos

no ha habido entonces nosotros lo que queremos saber es si es cierto que ya se ha avanzado mucho

si ya se ha decidido en el seno de san mamés barria en su caso

cuál ha sido la respuesta de la federación porque evidentemente los trámites no son trámites cortos son trámites que requieren un tiempo no solamente está la solicitud después hay que presentar un expediente se tiene que decidir evidentemente

hay que intentar si se quiere organizar ser de los mejores posicionados para que nos otorguen quisiéramos que nos contestara a estas preguntas y ver

le voy a ser sincero desconozco si existe alguna iniciativa

que usted ha planteado y si existe yo no estoy en la pomada

y todo lo que sé sobre este asunto es lo que he leído en dos medios de comunicación vizcaínos

que es una entrevista que el correo publicó con el presidente de la federación española de futbol

en la entrevista el periodista le planteaba esta pregunta al señor rubiales

si el athletic lo pide y luego empezaba a cantar las bondades de san mamés como un campo fantástico este estadio es un referente ahora mismo en modernidad

y añadía hay otra cuestión de mucho peso la historia del athletic que es muy importante en españa y en europa

es un referente en españa y en el mundo y cierro comillas porque

el pasado catorce de mayo después de que se disputaran las finales europeas de rugby en san mamés esas que tan buen resultado tuvieron en ella

afirmaba aunque no citaba ninguna fuente reconocible decía bilbao se ha revalorizado y los mismos socios de san mamés barria

retoman decía una idea vieja que no es otra que presentar la candidatura a albergar en un porvenir no muy lejano una final de la

que ya sondearon con la federación española años atrás y añadía bilbao quiere más y en su punto de mira emerge organizar

de la europa ligue y en el siguiente párrafo matizaba

gestionar y convencer a la federación española de futbol que es la que tiene que presentar sus candidaturas al organismo europeo

pero siempre hemos presumido de tener la ambición de mostrar nuestra identidad nuestra cultura nuestros paisajes nuestro modo de ser y vivir nuestra forma de trabajar

como atrayendo a visitantes internacionales tenga esa visita un objetivo cultural económico o y es lo que le puedo indicar

le confieso insisto que lo que sé sobre esta posibilidad es la que he leído en los medios de comunicación y si tiene usted alguna otra información le agradecería que me la hiciera llegar

con interés en cualquier caso gracias por su interés y por su iniciativa eskerrik asko zupiria jauna

señor consejero fundamentalmente gracias por la sinceridad porque información

y fíjese que yo pensaba que sí que nos la iba a dar pero

cuando nosotros nos planteamos primero preguntar cómo estaba la cuestión

para apoyar para que se empiecen las gestiones para que al final conseguir algo que evidentemente yo creo que nadie si no existe como le decía un interés partidista de no darle

pues creo que los beneficios de todo tipo

evidentemente negar la bondad de esa iniciativa no sería posible sí le agradezco bueno pues hoy usted aquí no haya dicho como se dijo en la diputación foral de bizkaia que ya llegábamos tarde como allí se dijo que ya llegábamos tarde pues claro señor consejero pues yo pensaba pues entonces es que el tema es que estarán muy avanzado estará ya muy avanzado y ya habrá una serie de porque es verdad como le digo que cuando nosotros nos planteábamos esta iniciativa uno busca mira y teníamos la misma noticia que usted

de la celebración de las finales europeas de rugby

que ponía de manifiesto este interés pero de formular gestionar y convencer a la federación española para presentar las candidaturas y yo le decía que el otro día cuando esto se preguntó se vino a decir que se requería estrategia trabajo trabajo continuado relaciones internacionales con lo cual

si está hecho que evidentemente el gobierno vasco como le digo como uno de los

debiera decía usted que no está en el secreto pues debiera de estar en su caso en el secreto en la pomada llámelo usted

es verdad se lo decía no es sencillo por ejemplo el año pasado cuando múnich que quiere albergar la final del dos mil veintiuno

el año pasado presentó ya la solicitud y tiene que presentar el expediente le estoy hablando para dentro

si queremos albergar una bueno hay que contar con que los plazos

el año que viene entonces se tiene que hacer un procedimiento que previamente se tiene que decidir en san mames barria que después se tendrá que decidir en su caso solicitando la federación que la federación lo tiene que presentar

de que se cumplen todos los requisitos no solo del campo porque lo que dijo el señor rubiales de las bondades no es publicidad

es uno de los mejores campos europeos y más bonitos con lo cual creo que como campo como ciudad

euskadi está perfectamente preparada para albergarlo pero para eso como le decía es necesario es voluntad política es necesario empezar los trámites

muy avanzados y que hoy usted aquí nos iba a poder decir exactamente qué es lo que se había hecho

pero bueno en cualquier caso seguiremos y desde luego creo como le decía como es una iniciativa contra

en contra creo que todas las instituciones y todos los partidos políticos estaremos ahí para que en su caso algo que transciende de lo deportivo

llanos andrea efectivamente el gobierno vasco es una de las entidades accionistas de san mames barria que le recuerdo

que se creó para apoyar la financiación del nuevo estadio

los socios institucionales cedieron en exclusiva al athletic la responsabilidad de la gestión y la explotación de san mames

pero le insisto y repito que si surge alguna posibilidad en ese sentido el gobierno la analizará siempre que se ha planteado alguna oportunidad de atraer a la comunidad autónoma vasca algún acontecimiento de alto nivel deportivo

que de él podría derivarse un bien relevante para la comunidad autónoma vasca el gobierno vasco se ha comprometido

y apoyaremos cuantos eventos resulten de interés económico deportivo cultural o social para la promoción internacional de euskadi y para beneficio de su actividad económica o para el disfrute de su ciudadanía así lo hemos hecho hasta ahora usted

que se disputaron en mayo de dos mil dieciocho en san mamés podemos citar también el próximo mes de mayo en vitoria se celebrará

de la euroliga de baloncesto que surgió como consecuencia de una iniciativa que adoptó el baskonia

esta posibilidad en este sentido también le anticipo

que organizaremos las instituciones vascas y que es consecuencia directa del reconocimiento internacional que tiene

aceptada en el plano internacional como una federación más se me ocurre que

logremos el reconocimiento internacional de la federación vasca de fútbol que hemos impulsado quizás sería más fácil que planteáramos esa solicitud a la federación vasca

lo único que necesitamos es ese reconocimiento por parte de la uefa y nos vamos a

por lo tanto insisto en que cualquier posibilidad que se nos plantee y merezca la pena ser estudiada y apoyada

o desconocimiento de momento no contamos con ninguna iniciativa eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako

arduradunak identifikatzeari ekin zion a consecuencia de aquella identificación se abrieron dos expedientes sancionadores por entender que en su proceder hubo

de la concentración no comunicada ya se resolvió por pronto pago el segundo expediente acaba de incoarse acaba de iniciarse su tramitación y el motivo es obstrucción a la autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones beraz ubera

señora ubera todo sirve para hacer demagogia está usted diciendo que todo sirve para hacer demagogia

hitz egiteagatik eta gainera usted aquí habla de que la formación que les falta formación que cómo tiene que ser la actitud le he dejado claro que el expediente

de aquella concentración no comunicada uno de ellos fue precisamente porque no estaba comunicada la persona que se hizo responsable resolvió por pronto pago ese expediente la segunda persona que fue identificada por obstaculizar por obstruir la labor de la

un expediente sancionador por tanto regulado perfectamente y por tanto en un procedimiento que acaba de iniciarse cabe toda la clase de

definitiva pero vuelvo a insistir el expediente no se ha abierto ni por hablar en euskera ni por solicitar que se hable en euskera

no intente confundir no intente confundir ni mezclar las cosas porque está meridianamente claro y como digo la persona que considera que no ha sido así está en un procedimiento que es garantista por tanto que alegue presente las pruebas recurra bueno afortunadamente contamos con esos procedimientos que nos dan las garantías

insisto no hagan pedagogía no un uso del euskera que no corresponde eskerrik asko

gracias señora presidenta señor consejero hace casi un año el veinte de febrero de dos mil dieciocho aprobábamos en esta cámara una moción por unanimidad

y funciones del observatorio turístico de euskadi junto con los agentes del sector y la mesa del turismo en el marco del plan estratégico turismo comercio y consumo dos mil diecisiete dos mil veinte también le instábamos a que informe al parlamento principalmente a los grupos de la cámara antes de cuatro meses

que dote al observatorio turístico de euskadi de los medios técnicos humanos necesarios para dar respuesta

competitiva del turismo también instábamos a que el observatorio incluya indicadores necesarios

más diversificado desde el punto de vista territorial y más sostenible desde la perspectiva de su impacto social y ambiental y por último le decíamos que

en tanto en cuanto entren en vigor esas nuevas estructuras que se van a diseñar

modelo de observatorio turístico de euskadi y nos gustaría saber cómo ha dado cumplimiento a este acuerdo aprobado por unanimidad en esta cámara eskerrik asko

trabajo con mucho trabajo tanto que no sé si voy a ser capaz de explicarlo en estos cuatro minutos que tengo de intervención y le pido disculpas si parezco una metralleta hemos creado el órgano estadístico del departamento aprobado en sesión de consejo de gobierno el dieciocho de junio de dos mil dieciocho este órgano ya actualiza y publica la información estadística del departamento ibiltur familitur frontur

y actividades de las oficinas de turismo además de otros indicadores del sector comercial

estadística además este órgano está trabajando en el desarrollo de un novedoso monitor de inteligencia turística de euskadi que incluye las siguientes secciones demanda turística movimientos turísticos gasto turístico oferta turística transporte comparativa con otras comunidades autónomas datos económicos del sector del turismo perfil del turista

se ha publicado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho basquetour además de otros estudios que obviamente ha continuado haciendo reputación escucha activa y en línea con el objetivo del departamento de desarrollar un observatorio turístico para las necesidades actuales basquetour ha realizado dos proyectos relevantes

la digitalización del destino lo cual redunda en la producción de datos se inició en febrero y sus resultados se presentaron

entre sus objetivos está obtener datos estadísticos del comportamiento del visitante en destino la colocación de balizas y publicación de la app se hizo para octubre de dos mil dieciocho

en diciembre y finalizará este mes de febrero además para facilitar el acceso a los estudios producidos por basquetour hemos renovado la página web el veintiuno de junio de dos mil dieciocho se hizo el volcado de datos y la publicación en abierto del sitio web bajo el dominio wwwbasquetour berriaeus el dominio

y es donde pretendemos volcar la página por razones de visibilidad pero la migración de momento no ha sido posible por problemas técnicos en los servidores de la spri por eso mantenemos la doble página actualizadas ambas a la espera

y por fin como le anuncié entonces realizamos un diagnóstico con segittur

un estudio diagnóstico para la puesta en marcha de un sistema de inteligencia turística partiendo de un análisis exhaustivo

ha seguido distintas fases hasta que el veintisiete de septiembre pasado se hizo entrega de los resultados del análisis y un catálogo de fuentes se han identificado sesenta y ocho fuentes de datos treinta y dos de entidades territoriales

para implementar el monitor de inteligencia turística de euskadi del que le hablaba antes pero en varios casos las fuentes propuestas requieren de un desembolso económico que debemos ajustar a nuestras posibilidades presupuestarias para lo cual nos serviremos del previsto análisis del retorno de las políticas públicas de la fundación que estamos en fase

sí señor consejero sabemos que han hecho cosas pero sí que es verdad que hemos recibido comunicación de muchos agentes del barullo que notan a la hora de buscar cosas y por lo tanto lo que entendemos

es que esto requiere de un orden de tener una estructura que sea ágil

y que puedan tener fácil acceso y eso parece

no se da todavía se mantiene alguna pantalla en basquetour del observatorio que no lleva a ningún sitio

hay cosas y no décimos que no han hecho nada pero nos parece que es un

del sector estuvimos un día trabajando para buscar y llegar a la información y créame que no es fácil por lo tanto

que esto requiere de un orden y además nos decía el órgano estadístico bueno ustedes hicieron el decreto de

su departamento es un departamento troceado de otro y no tenían órgano y

para mantener la estadística del gobierno pero no aporta lo que realmente no

entendemos que debe ser un observatorio que sería para que los agentes del

identifique las tendencias del turismo que nos identifiquen las demandas que gestione de manera inteligente la información el conocimiento

no está nos ha dicho de algunas dificultades que no he llegado a captarlas por esa velocidad que usted ha dado a la intervención que ya las leeré

y falta profundidad en algunas cosas y que hay que hacer una herramienta que pueda estar al alcance de todos los agentes y que sea ágil visible y que realmente sirva yo

que yo creo que tiene unos objetivos muy importantes

se está haciendo y se ha hecho una herramienta muy potente y a eso tenemos que llegar señor consejero eskerrik asko

gracias señora presidenta señora lópez de

la hemos renovado ya la cargamos en junio pretendemos ponerla obviamente en el lugar de mayor visibilidad con la dirección antigua

los servidores yo tampoco lo entiendo mucho la verdad los servidores tienen algún problema de lenguajes y por lo tanto no se adecuaban

y por eso mantenemos las dos páginas web en las dos direcciones que le he dicho y en el nuevo hay una pestaña específica para estudios porque efectivamente en la página vieja para buscar los estudios por ejemplo hay que ir al buscador y es mucho más engorroso esta es

monitor de inteligencia turística que abarca muchas más variables que todavía está en fase beta
pero que está en camino de crear eso que usted decía eskerrik asko retortillo jauna gai zerrenda agortu dugunez